proposición de ley de reforma de la ley ocho barra mil novecientos ochenta y seis de veintiséis de junio de iniciativa legislativa popular esta ley

de euskadi ha pasado más de un cuarto de siglo desde que se aprobó una ley que en nuestra opinión se ha demostrado durante todo este tiempo excesivamente

en la vida parlamentaria y que en todo caso en nuestra opinión se ha quedado

es una ley claramente insuficiente y obstaculizadora para atender y facilitar el deseo actual de participación política de los ciudadanos

a los nuevos tiempos durante los últimos tiempos la ciudadanía ha expresado de un modo u otro su descontento con las imperfecciones y las estrecheces del sistema democrático y ha mostrado su deseo de participar directamente en los asuntos públicos nuestra obligación y lo que nosotros pretendemos con esta proposición de ley es facilitar

que son de su interés de ahí nuestra intención con esta proposición de ley de mejorar los instrumentos ya existentes para acercar las instituciones a los ciudadanos y propiciar o facilitar su participación en los asuntos públicos que les conciernen esta propuesta de reforma de la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular pretende facilitar que los ciudadanos y los grupos sociales tomen parte en la función legislativa haciendo más sencillo y menos restrictivo

iniciativas que luego puedan ser debatidas y votadas finalmente aquí legezko proposamen honen helburuak hurrengoak dira politika hiritarrei

hiritarren partehartzea erraztu se trata por lo tanto de acercar la política a los ciudadanos regenerar y ensanchar la democracia facilitar la participación de los ciudadanos en la vida parlamentaria suprimir los obstáculos existentes para que los ciudadanos participen parlamentaria que los ciudadanos entiendan que el parlamento es sobre todo suyo no un lugar extraño o lejano a sus intereses y propuestas o reivindicaciones es decir el parlamento vasco debe ser un medio un canal para que los ciudadanos puedan plantear sus reivindicaciones no un obstáculo obviamente para lograr estos objetivos esta proposición de ley

habrá que proponer otras reformas y otras medidas y habrá que corregir determinadas actitudes de los representantes políticos en todo caso es una proposición de ley suficiente en nuestra opinión sí muy necesaria proponemos modificar el artículo uno de la ley para ampliar el abanico de ciudadanos que puedan ejercer la iniciativa legislativa popular de modo que tengan derecho a ejercer la iniciativa los ciudadanos que sean mayores de edad y estén inscritos en el padrón de alguno de los municipios del país vasco

tener la nacionalidad española tener la nacionalidad de algunos de los estados miembros de la unión europea

en materia de extranjería proponemos modificar el artículo dos de la ley para excluir de las materias que se excluyen de la iniciativa legislativa popular aquellas referidas al régimen

del régimen electoral vasco proponemos modificar el artículo tres de la ley para reducir el número de firmas necesarias para presentar una ilp si en la actualidad se piden treinta mil planteamos que basten

para concluir que la ley vasca actual es excesivamente restrictiva y obstaculizadora existe un indisimulado recelo ante este elemento de democracia semidirecta

proponemos además incorporar en este artículo tres de la ley algunas otras cuestiones de interés proponemos modificar el apartado dos del artículo cinco

inadmisibilidad de la proposición de modo que el hecho de que exista en tramitación en el parlamento un proyecto o proposición de ley que verse sobre el mismo objeto de la iniciativa popular no sea causa de que la ilp no sea admitida y que tampoco sea causa de inadmisibilidad

aprobada por el parlamento en la misma legislatura que verse sobre idéntico objeto que el de la ilp proponemos también modificar el artículo ocho y el apartado uno del artículo nueve proponemos modificar el artículo once para permitir que el debate de la iniciativa se inicie con la defensa de la iniciativa en pleno

y para permitir que participe también un representante de la comisión promotora tanto en ponencia como en comisión para fijar su posición respecto de las propuestas y enmiendas del resto de grupos proponemos modificar el artículo trece para que la mesa del parlamento vasco pueda

de la recogida de firmas a petición de la comisión promotora vía disposición adicional pedimos que pueda garantizarse la posibilidad de presentar la suscripción de apoyos a las iniciativas legislativas populares a través de la firma

para lo que se dictarán las instrucciones pertinentes que garanticen la eficacia y la seguridad de este medio telemático por lo tanto y en resumen planteamos

las firmas necesarias para poder presentar una ilp en el parlamento vasco facilitar la utilización de la firma electrónica en la suscripción de apoyos a la correspondiente ilp que se pretenda plantear y defender que los promotores de la ilp tengan voz durante el proceso de debate parlamentario tanto en la presentación de la iniciativa en pleno como incluso en el debate de las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios tanto en la ponencia

reducir las causas que permiten que una ilp no sea admitida y finalmente ampliar los temas que puedan ser objeto de la ilp entre otras aunque estas son

que upyd realiza si finalmente se toma en consideración esta proposición de ley estamos seguros que las aportaciones del resto de grupos y el trabajo en ponencia

el texto definitivo esperamos en todo caso que las enmiendas del resto de grupos no vayan

o restringir lo que upyd propone sino en la línea de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida parlamentaria esta es por lo tanto la propuesta de upyd y espero que cuente con la aprobación del resto de grupos para que de ahora en adelante podamos llegar al mejor texto posible como digo

bien mi grupo va a posicionarse a favor de esta iniciativa que nos trae el señor maneiro tenemos una ley de mil novecientos ochenta y seis de iniciativa legislativa popular y es posible

una revisión quizá no en el sentido estricto de lo que propone el autor de la iniciativa pero sí a la vista de algunas dificultades o

enmendaremos y desde luego pues aportaremos también nuevos planteamientos a los que aparecen en la propia ley

el grupo proponente además señor maneiro veo que

el protagonismo de la reforma de la iniciativa legislativa popular al propio partido nacionalista vasco y al propio gobierno por dos veces el gobierno dice en su criterio

en el programa electoral del pnv o en el propio programa de gobierno señor maneiro tengo que reconocer que pocas veces ha redactado el gobierno un criterio tan ilustrativo y auto justificativo pocas veces con tanto detalle

la enhorabuena porque ha estimulado al gobierno a hacer un criterio ilustrativo y

iniciativa legislativa popular en la cámara es correcto y además es oportuno

hacerlo además cuando la sociedad ha avanzado tanto reclama fórmulas renovadas mejoradas de

es contribuir a adecuar este instrumento a la propuesta legislativa y desde luego en ese sentido tenemos que

y debe ser admitido como oportuno como necesario ese planteamiento

han cambiado tanto han avanzado tanto han mejorado tanto y tenemos que ser

la concepción y la consideración de los instrumentos de participación ciudadana ha avanzado desde luego mucho en este cuarto de siglo

se mueve en una incluso terminología y en unos conceptos ya muy superados y mucho mejor definidos en la actualidad o sea que en ese sentido esa propia

la proposición de ley que presenta upyd pues sigue

su rechazo o recelo permanente con el régimen foral y con la realidad política institucional de los territorios históricos de alguna manera hemos visto que en alguna de sus enmiendas

sepa usted también que los territorios históricos que las juntas generales a través de sus correspondientes normas forales de participación o de iniciativa legislativa

también los territorios históricos también los órganos forales también las juntas generales facilitan el acceso

con sus iniciativas populares eso está ahí eso se recoge así que una vez más hay que ver que tenemos que avanzar en la articulación y en la mejora en la superación

la iniciativa legislativa popular vasca pero también tenemos que reconocer que hay esos ámbitos de participación

que desde luego están ahí también se podrán adecuar seguramente

ante los órganos forales establece también en álava esa regulación prácticamente a la vez de que la que constituimos en el parlamento vasco así que en ese sentido también hay que saber

funciona también a ese nivel en fin si los territorios históricos tienen sus competencias en los órganos forales

las propuestas normativas populares y en ese sentido no hay que tener recelos y no hay que obsesionarse con

y los órganos forales y las competencias forales en cualquier caso la iniciativa está ahí

la revisión votaremos a favor iremos en la línea desde luego en el trabajo parlamentario de mejorar la propuesta que nos ha hecho el señor maneiro y

legebiltzarkideok egun on guztioi los socialistas vascos

abordamos el reto de poner los medios para gobernar con la gente

nos comprometimos y seguimos comprometidos con la idea de elevar la calidad democrática de nuestro sistema que pasa entre otras cosas por mantener un diálogo permanente entre la administración y la ciudadanía en coherencia con estos principios vamos a apoyar la toma en consideración

de veintiséis de junio de iniciativa legislativa popular una herramienta y no la única para conseguir los objetivos que nosotros nos planteamos

hace ahora veintisiete años el estado español vivía una democracia incipiente

que devolvió la legalidad democrática a nuestra ciudadanía en todos estos años han ocurrido muchas cosas que han cambiado absolutamente la configuración de nuestra sociedad

de las nuevas tecnologías como elemento básico de comunicación entre las personas

a la necesidad de adaptar las reglas de juego democrático a las nuevas exigencias de los ciudadanos y ciudadanas la ciudadanía reclama más participación en la vida política

en cada convocatoria electoral a estos hay que abrirles cauces de escucha permanente

impulsó medidas y creo herramientas dirigidas a conseguir el objetivo de una administración más transparente y participativa la iniciativa más importante en este sentido fue la puesta en marcha del portal irekia mediante el cual la ciudadanía

en su gestión haciendo propuestas irekia fue pionera en españa y reconocida internacionalmente esta iniciativa

es decir dar a conocer las informaciones los datos las decisiones y las intenciones y planes sin filtros que los ciudadanos puedan opinar reflexionar aportar criticar valorar

no quedarse solo en la opinión sino tener la oportunidad de realizar un trabajo de colaboración con el gobierno que el ciudadano pueda participar en las políticas que proponga el ejecutivo

colaboración era la tercera premisa que

propias informaciones directamente con la fuente y que se conviertan en ciberperiodistas elaborando sus propias opiniones

a través de la red a esta iniciativa había que añadir otras en el mismo sentido de fortalecer la transparencia y participación ciudadana como fue open data perfil del contratante perfil de empresas adjudicatarias con administración pública vasca y otras

como es el calendario legislativo y que el actual gobierno está decidido a mantener y otras como el código de ética y buen gobierno que este gobierno

esta legislatura desde la oposición seguimos comprometidos con los mismos principios y por ello hemos presentado diversas iniciativas como es la proposición de ley reguladora

y de su régimen de incompatibilidades cuya ponencia ya está trabajando y la proposición no de ley en relación con las modificaciones reglamentarias relativas a la mejora de transparencia la agilización de los trabajos y la participación en la cámara vasca aprobada

recientemente y pendiente todavía de constituirse la ponencia de trabajo bien con este bagaje abordaremos el debate tanto en ponencia como en comisión de la proposición de ley

que hoy tomaremos en consideración nuestro trabajo las enmiendas que elaboremos irán encaminadas a que la modificación de la ley

establezca cauces para el debate entre los promotores de las iniciativas legislativas populares y los grupos parlamentarios y se permita el contraste y la argumentación

gabe todo para el pueblo pero sin el pueblo aquel fue

y es hoy defendido por quien trae aquí esta iniciativa existen grupos políticos aquí representados cuyo modelo de representación política y de acción política

concepto que nada tenía que ver con la democracia participativa pero que puede llegar a cubrir con un alo de participación política lo que en ningún caso es un proceso democrático radical

así lo que hace unas décadas era una apuesta de la izquierda transformadora para empoderar a la ciudadanía

con los poderes económico financieros hoy la derecha y esa falsa izquierda utilizan los conceptos de participación ciudadana con el fin de convertir un concepto radical

haciendo que la propia población se aleje aún más de la participación política

la participación o no de la ciudadanía en la política nunca debería plantearse sobre el nivel político administrativo

y no el otorgar a la ciudadanía la capacidad política de poder transformar su realidad

la participación política empieza desde abajo desde lo común desde la propia calle de cada uno y una en la política de barrio de pueblo o de ciudad

pero esos procesos les dan miedo lo que hoy se propone no

el grupo mixto hoy votarán a favor de la toma en consideración todos los grupos representados en esta cámara ninguno se opondrá y no lo harán porque saben que nadie cambia con la propuesta de upyd

y somos los y las que aquí nos sentamos quienes pararán o no cada una de las iniciativas legislativas que provengan de la propia ciudadanía nada cambia

se trata de números no de participación se trata de trámites no de participación se trata de blanquear la fachada

en definitiva se trata una vez más de cambiarlo todo para no cambiar nada tampoco en esta ley

hori da herritarrei adarra jotzea eso no es participación

como también lo es decir que irekia es participativo como se tomó el pelo también a la gente en este mismo parlamento cuando por la puerta de atrás

una iniciativa que provenía de las juntas generales de araba con el fin de no permitir la utilización de la técnica del fracking dejando fuera por cierto una ilp que provenía de la plataforma fracking ez araba

pues el que ustedes bien conocen enmendaron toda la ley pero no tocaron el punto presentado a debate contraviniendo la opinión del propio letrado del parlamento

sus amigos los lobbies energéticos a quiénes dirían ustedes que representaron en esa ocasión para quienes trabajan ustedes para las empresas energéticas o para la ciudadanía

sobre el criterio que nos presenta el gobierno vasco se recogen varias críticas

y no puedo estar más que conforme con ello en definitiva no hablamos de qué modelo de participación nos dotamos ni de cuáles son los cauces reales para democratizar la toma de decisiones políticas sino que hablamos de números y de criterios

hablamos de un proceso hablamos de mecanismos de participación de criterios y de otros conceptos muy interesantes que se deben plantear no únicamente para le ley de participación sino que debe servir para todas las políticas en general por ejemplo

para los recortes para las basuras para la modificación de entes locales para los nuevos estatus políticos las relaciones con países vecinos etcétera

de preguntar a la ciudadanía y que no debería dar miedo hacerlo sin tener que ir a fechas como la del dos mil veinte demagogia naizela esango duzue

pero en definitiva lo que he intentado explicar hoy y se expresa con la abstención de mi grupo ante esta iniciativa es todo el poder para el pueblo

para poder demoler este sistema que en definitiva es el culpable de que hoy estemos hablando de la participación ciudadana en la política y todavía no se esté ejerciendo la misma

popular por su apoyo y espero que finalmente el grupo nacionalistas vascos a pesar de que no ha utilizado su turno a favor vote a favor de esta iniciativa porque los objetivos son evidentes ya digo acercar la política a los ciudadanos

la democracia facilitar la participación de los ciudadanos en la vida parlamentaria suprimir los obstáculos existentes para que los ciudadanos participen en la vida parlamentaria y que los ciudadanos entiendan que este parlamento es suyo y no un lugar extraño

de la ciudadanía estos son los objetivos y por lo tanto agradezco a los grupos que finalmente van a votar a favor de esta iniciativa evidentemente del contenido hablaremos después creo que

estos objetivos hay algunas propuestas que para nosotros serán irrenunciables como la reducción de las firmas necesarias como la utilización de la firma electrónica como que los promotores puedan participar tomar la palabra en este pleno y puedan defender también sus iniciativas o posicionarse

en la comisión correspondiente o en la ponencia o reducir las causas que permiten que una ilp no sea admitida o ampliar los temas

estoy seguro que las enmiendas del resto de grupos si finalmente se toma en consideración cosa que espero mejoren el texto definitivo evidentemente

demoler el sistema es lo que ha dicho el representante

demoler el sistema democrático en el que no creen y por eso se posicionan en contra de los objetivos que tiene esta proposición de ley en contra de acercar la política a los ciudadanos en contra de ensanchar la democracia en contra de la participación de los ciudadanos en fin

no tan curioso ni tan extraño a lo que han venido haciendo en los últimos tiempos el representante de eh bildu a las decisiones

elegido democráticamente lo define como ustedes hacen lo que les da la gana es decir desprecian por lo tanto la democracia desprecian el sistema

dice que nada cambia sin embargo lo que ellos pretenden es ya digo demolerlo todo este es el respeto de eh bildu a los procedimientos democráticos

tal como ustedes acaban de decir en fin entiendo que convencer a eh bildu de que tiene que aceptar los procedimientos democráticos que imposible a mí me queda únicamente agradecer a los partidos políticos democráticos que son creo los que van a votar favorablemente a esta iniciativa el voto favorable y que en todo caso después de la toma en consideración nosotros estamos dispuestos abiertos a escuchar las enmiendas que puedan plantear

el texto definitivo esta iniciativa evidentemente no es suficiente hay muchas cosas por hacer algunas cosas se han hecho efectivamente en los últimos tiempos esto no es suficiente

nosotros anteayer mismo hemos registrado una proposición no de ley para pedir al gobierno vasco una ley de transparencia una ley de transparencia que tenga como objetivo asegurar el derecho a la información de la ciudadanía otro paso más por lo tanto

para perfeccionar la democracia y para ensanchar la democracia no es suficiente con esto hacen falta más pasos pero en todo caso creo que es un paso necesario
nada más y gracias otra vez a los grupos que votarán a favor de esta proposición eskerrik asko maneiro jauna

que un representante elegido mediante el sufragio universal

yo creo sinceramente que el

es mucho más difícil de manipular que una asamblea de pueblo o de barrio y ustedes señores de eh bildu que son especialistas en eso

absolutamente los términos confunden absolutamente los términos no dan valor a la democracia representativa democracia representativa que logró tantos años tantos siglos conseguir

y ustedes la tiran por la borda tiran usted ha hecho hoy aquí señor lópez de

pensando que estaba usted defendiendo la democracia participativa pues no nosotros pensamos

son dos planteamientos que deben ser complementarios y uno no debe anular al otro

es que la democracia representativa debe ser anulada por la supuesta democracia participativa que ustedes abogan

se formula que no tiene reglas que simplemente según su experiencia y su forma de trabajar lo que hace es manipular tanto

a los participantes en todas estas asambleas por eso creo sinceramente que ustedes todavía no entienden el valor de la democracia representativa

estar sentados en esos escaños no le dan valor y nos confunden

nosotros creemos que hay que avanzar y lo he dicho en mi primera intervención hay que avanzar para que las personas

participe en política hay que abrir nuevos cauces lo decía también en mi primera intervención la sociedad

ha avanzado muchísimo en los últimos veinticinco treinta años tenemos que ajustarnos a eso pero eso insisto no quiere decir

es un valor en sí misma tiene un valor por sí misma

realmente de democracia países democráticos es aquellos en los que la democracia representativa se basa en eso en el sufragio universal

es mucho más difícil manipular un sufragio un voto

que una asamblea de barrio o una asamblea de pueblo como ustedes pretenden muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko

a repartir los carnés de demócrata o no

los demócratas qué representan los demócratas y qué no representamos en este caso la bancada de euskal herria bildu el problema es que ustedes siguen mintiendo y siguen mintiendo también a la ciudadanía esa ciudadanía que está

de todo el sistema representativo de esa casta política que ustedes representan de todos los sistemas de cómo controlan el propio sistema democrático representativo

y que ustedes dicen abanderar esos poderes financieros esas empresas energéticas en las que luego ustedes acaban trabajando por y para ellas

un salario fijo ese es su modelo lo que yo he intentado decir desde aquí es que y hay que abrir la democracia en el ámbito local cuando hablamos de participación no podemos hablar de firmas lo que tenemos que hablar directamente es de cuáles son

cuál es la política participativa que se puede poner en marcha desde las instituciones más cercanas a la ciudadanía

o incluso los barrios las calles la política del día a día y de eso tenemos que hablar pero eso es de lo que ustedes nunca quieren hablar prefieren traer una modificación de ley

modificar o no y permitir o no la participación ciudadana en la que es la política legislativa pero que no va más allá ni aporta absolutamente nada al debate de la democracia participativa modelos de democracia participativa

euskal herria bildu los hay y ya se están haciendo

tenían procesos participativos abiertos y ahora son la mayoría de los pueblos que están realizando ya algún proceso participativo y para eso qué hay que hacer medios formación

dinero porque también hay que dar dinero y sobre todo tener la valentía de aceptar cuál va a ser el resultado de ese proceso participativo

euskal herria bildu ya desde el principio antes de venir ya a esta institución realizamos un proceso participativo incluso para desarrollar nuestro programa electoral
lo hicieron ustedes no isiltasuna mesedez

euskal herria bildu trae a todas las comisiones a muchos más agentes sociales que ustedes y eso se está demostrando en esta legislatura se está demostrando en esta legislatura ustedes

no tampoco estamos trabajando con grupos que se dedican a la participación ciudadana isiltasuna mesedez
estamos trabajando con grupos que se dedican a la participación ciudadana para desarrollar y modificar esta ley tampoco porque no porque simplemente realizan un trabajo alejado de la ciudadanía creen que modificar los criterios es lo que les acerca a la ciudadanía

está en que ustedes no tienen ningún modelo de participación eskerrik asko

sí gracias presidenta interpelamos hace dos semanas al consejero de empleo

en la construcción del nuevo san mames decíamos en aquella ocasión que hemos tenido conocimiento a través de un medio de comunicación y por otras vías

y para la cual los ciudadanos vascos hemos aportado millónes de euros

y siete días a la semana por novecientos setenta euros un ritmo de trabajo por llamarlo de algún modo que solo puede denominarse como de esclavitud y que en todo caso incumple el convenio del sector en bizkaia así como cualquier normativa sobre seguridad laboral

de trabajadores que estarían o que habrían estado bajo esas inaceptables condiciones laborales se han venido invirtiendo muchas más horas de las fijadas por ley

y no sé si siguen estando por debajo de lo fijado en los convenios colectivos y las horas extras no aparecen reflejadas en las nominas lo cual significa que o bien no son abonadas

con el consiguiente fraude fiscal que eso conlleva es un asunto que ya ha sido tratado en las juntas generales de bizkaia y es un asunto que ha causado

de crisis económica de empeoramiento de las condiciones laborales de injustas reformas laborales de trabajos precarios de sueldos indignos de abusos laborales de accidentes laborales de eres

en fin de precarización general de las condiciones laborales y del empleo y nosotros como representantes públicos gracias a esta democracia representativa que

y ágil no solo para evitar que determinados abusos se produzcan y en este caso me refiero a irregularidades e ilegalidades evidentes sino también para hacer ver a los ciudadanos que efectivamente no podemos consentir y que no vamos a consentir

por eso pido a todos los grupos de la cámara el apoyo a esta iniciativa que por lo demás no deja de ser ni puede ser otra cosa que de obligado cumplimiento de hecho creo que finalmente la transaccional que hemos firmado

no se puede pedir no podemos consentir que se produzca ni un solo abuso

y allí donde se produzca debemos rápidamente erradicarlo y lanzar un mensaje contundente de rechazo claro de rechazo diáfano y de deslegitimación de esas practicas yo le interpelé hace dos semanas al consejero

su respuesta como suele ser habitual en estos casos el consejero defendió la actuación del gobierno y de la inspección de trabajo en este caso y dio ciertamente una serie

en la trascripción de la interpelación realizada señaló que desde septiembre de dos mil once se gira visita a la obra de construcción del nuevo estadio de san mames y añadía que las inspecciones son exhaustivas

se están adoptando los medios necesarios para velar por el cumplimiento de la normativa legal y laboral tanto en materia laboral como de prevención de riesgos laborales y añadía que existen en estos momentos algunos indicios de que pudieran no estarse aplicando las tablas salariales en tres empresas situación que ha sido denunciada y que se encuentra en tramites de comprobación en conclusión

ha venido actuando pero no parece que haya podido evitar que se hayan dado situaciones de esclavitud de abusos laborales y de incumplimientos

es que efectivamente no puedan darse ni repetirse ni en las obras de san mames ni en ninguna otra incumplimientos de la legislación laboral y pretenden lanzar esta moción un mensaje a la ciudadanía de que estamos dispuestos a tomar y que vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que estos incumplimientos

una moción a esa moción se plantearon dos enmiendas de totalidad

todo ello ha sido incorporado en esta enmienda transaccional que finalmente hemos firmado razón por la cual agradezco a los grupos que finalmente han firmado

el parlamento insta al gobierno vasco a que en el ejercicio de sus competencias y en lo referente a la ejecución de las obras públicas

de la legislación laboral y los convenios sectoriales ya que las instituciones públicas deben dar ejemplo

para que se controle de verdad de forma efectiva el cumplimiento de la normativa laboral y se eviten condiciones indignas y de inseguridad para los trabajadores de las obras públicas

e insta al gobierno vasco a aprobar la relación de puestos de trabajo de la inspección de trabajo en el consejo de gobierno

en el plazo de tres meses para poder cubrir las vacantes existentes a la mayor brevedad aunque efectivamente como les explicará el portavoz socialista parece tiempo más que suficiente tiempo excesivo incluso esos tres meses que se plantean en esa enmienda transaccional pero que hemos acordado tanto con el grupo socialista nacionalistas vascos en fin esta es la enmienda transaccional que finalmente hemos firmado estos son los objetivos de esta moción acabar con situaciones

con situaciones indignas con explotación laboral acabar con todas estas situaciones y lanzar un mensaje de exigencia al gobierno vasco a la inspección de trabajo y lanzar también el mensaje a la ciudadanía

representantes políticos no vamos a permitir que se produzcan abusos de este tipo ni ahora ni en el futuro gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta egun on guztioi efectivamente como ha

el señor maneiro el pasado cuatro de octubre se sustanció en esta cámara una interpelación presentada por él en el que se hacía eco

a raíz de una denuncia sindical referida a la emblemática obra

en dicha denuncia como bien ha dicho él se ponía de manifiesto el incumplimiento sistemático del convenio de la construcción en bizkaia con jornadas abusivas

y lo que decía en ese momento el señor maneiro

es cierto que en todas las obras cualquiera que sea su carácter público privado la administración debe estar vigilante del cumplimiento de la normativa

como en la observancia de la normativa referida a la prevención de riesgos laborales y esta vigilancia debe ser aún más intensa si cabe en el caso de que sea una obra pública como es esta

el gobierno vasco ostenta casi el diecinueve por ciento del capital ha aportado más de cincuenta millónes de euros y también otras instituciones

concreta y ha provocado un debate social sobre si ese tiempo era suficiente o no era suficiente porque a juicio de algunos una obra de tal envergadura exigía un tiempo mayor

tanto lo relativo a las condiciones de trabajo como a la prevención de riesgos tenga que cumplirse de forma rigurosa sin excepción

lugar a situaciones de inseguridad de explotación laboral o fraude en esa denuncia que usted se hizo eco

son así porque están en este momento en inspección tendrán la sanción correspondiente

en euskadi para la vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

la inspección de trabajo si uno va a la memoria de osalan de dos mil doce en la parte relativa a la evolución de accidentes con baja laboral se pone de manifiesto que en la misma en el año dos mil doce continúa esa tendencia y al iniciar en el dos mil nueve de descenso de accidentes con un trece por ciento menos

y en la construcción donde ha habido un once por ciento menos y los accidentes mortales se han visto reducidos en un veinte por ciento aunque es cierto que aumentaron en la industria en gipuzkoa en el sector primario en álava y en la construcción en bizkaia en lo relativo a la inspección de trabajo hay que señalar que la inspección de trabajo y seguridad social que cuenta actualmente con ciento tres efectivos en el año dos mil doce

actuaciones planificadas en el ámbito de las relaciones laborales ha tramitado la inspección de trabajo cuatro mil setecientos setenta y tres órdenes de servicio que han dado lugar a quinientos cuarenta y cinco requerimientos y doscientos cuarenta y dos infracciones revisándose más de siete mil contratos de trabajo

por qué he dado todos estos datos señor maneiro porque yo creo que de la misma forma que deberíamos denunciar cuando hay incumplimientos de la normativa laboral porque es verdad

decir que las instituciones no actúan también puede generar cierta alarma social y creo que es bueno que veamos y que demos los datos de que aunque

puede haber ocasiones de fraude ocasiones de incumplimiento es cierto que las administraciones están a raíz de ambas memorias si uno se lee ambas memorias las correspondientes al dos mil doce se ve que los funcionarios y las funcionarias están trabajando

el objeto concreto que dio motivo a su interpelación y a la moción de hoy también se están haciendo cosas yo creo que no podemos poner en duda que lo que aquí puso de manifiesto

con lo que se está haciendo como usted ha dicho yo no voy a reiterar todas las actuaciones que aquí se relató y que uno leyendo la interpelación puede revisar y percatarse de ellas hay un dato que yo creo que también nos tenemos que quedar que es que de las sesenta y siete empresas que están participando tal y como puso de manifiesto el consejero tres

yo sé que cualquier incumplimiento es grave porque estamos hablando de condiciones laborales de los trabajadores y porque en un estado de derecho ese tipo de situaciones no se deben permitir pero también compartirá conmigo que si realmente es así luego habrá que ver si esas tres

no es una mala foto es cierto que para los que están trabajando en esas tres empresas les da exactamente igual

estoy totalmente de acuerdo con usted pero creo que también tenemos que poner las cosas en sus justos términos

y yo creo que es importante que también demos un llamamiento aquí

en esta materia la responsabilidad y la concienciación es doble por una parte es imprescindible y desde aquí creo que todos debemos exigírselo que las empresas se sumen a las obligaciones relativas a las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo

de trabajo en la realización de evaluación de riesgos y planificación preventiva y en la formación e información de los trabajadores en prevención y riesgos de sus puestos de trabajo

una implicación de los trabajadores que deben de ser cumplidores de las medidas de seguridad laboral el señor consejero puso de manifiesto en esta cámara

la inspección de trabajo se había aplicado con especial rigurosidad

que esa misma rigurosidad se aplique siempre yo creo que es a lo que va dirigida la iniciativa

a una enmienda en la que a usted se le ha olvidado señor maneiro nosotros también hemos firmado

porque debemos dar ejemplo desde las administraciones públicas pero en las que no sean públicas también y siendo cierto esto

más allá de la vigilancia es cierto que las instituciones públicas como decía deben dar ejemplo de ese

como tendré ocasión de explicar después con arreglo a otra iniciativa

llegamos a un acuerdo en esta cámara en mayo y se reiteró en octubre precisamente en lo que se solicitaba al gobierno vasco era que fuera especialmente vigilante

en las contrataciones sin que se cumpliese esa normativa pública creo que ese mandato existió en ese momento creo que ese mandato con sus defectos o con sus fallos en un momento determinado se está cumpliendo que en caso de incumplimiento se debe estar especialmente vigilante pero creo

hemos firmado esta enmienda transaccional que esperemos que salga adelante
con el apoyo de todo los grupos nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

gracias presidenta buenos días lehendakari señorías estamos completamente de acuerdo

estamos de acuerdo en la oportunidad de la iniciativa y en sus contenidos de hecho eso se deduce claramente de una enmienda de adición que no pone en cuestión el texto previo

céntrica a la vista de todo el mundo emblemática por emplear el término que ha dicho el proponente

y por supuesto pues eso debe dar lugar lógicamente al análisis y al debate correspondiente que es de lo que venimos a hablar aquí por lo tanto completamente de acuerdo con la iniciativa

de aprobar la relación de puestos de trabajo porque claro a todo ese estado de cosas que aquí se ha descrito tanto por el proponente como por la señora llanos efectivamente

con la mayor intensidad y de la manera más eficaz posible las capacidades y las potencias que tiene la inspección de trabajo pero claro resulta que nuestro grupo

en el mes de junio preguntó al consejero del ramo precisamente

y el señor consejero dijo que para julio se aprobaría porque quiero recordar señorías

en el consejo de gobierno hasta donde yo sé y si la información que poseo es correcta en fin salvo que no sea así esto parece ser que es el estado de cosas en cuanto a la plantilla de la inspección de trabajo que como vemos en este punto es esencial es nuclear para atender esta problemática de la que estamos hablando

planteó que esto para julio se resolvía bueno julio ha pasado estamos a mediados de octubre

es decir no puede tardar tanto una rpt de la inspección de trabajo

cuyos servicios son tan necesarios como se está viendo ahora en ser aprobada es que ni la antorcha olímpica anda dando tantas vueltas es decir eso se tiene que aprobar ya

por qué los socialistas después de plantear en nuestra enmienda de adición un mes que nos parece plazos más que suficiente para un trámite de esta naturaleza aceptamos que sea en tres

y en segundo lugar porque aunque hubiera salido triunfante la tesis de que se haga en un mes

a mí me gustaría que alguien del grupo parlamentario nacionalista que es quien tiene la palabra en este punto explicara por qué se necesitan tres meses pues claro que es un tiempo excesivo

la importancia que tiene que se despliegue la plantilla de la inspección de trabajo en su totalidad y que sepamos también a partir de esa relación de puestos de trabajo qué vacantes existen y cómo cubrirlas

si hay que poner a la inspección de trabajo en esta y en todas las obras públicas o privadas pero esencialmente hablamos de las públicas porque es irritante que promovidas por los poderes públicos puedan estar burlándose

de las normas y de los derechos de los trabajadores por eso tratamos de poner remedio de manera que celebrando de nuevo el acuerdo y la disposición de los grupos a la transacción

lleva ya mucho tiempo demorándose y desde luego nos gustaría saber realmente qué responde cuál es la razón de ser que pueda ser comprensible por parte de todos de por qué se puede tardar tanto tiempo nada menos que tres meses cuando el señor consejero planteaba que para julio estaría

sala esta cámara conociera a qué se debe una demora de este tipo en un servicio tan importante como es la inspección de trabajo termino pues diciendo que celebramos el acuerdo

y por lo tanto nada más espero que alguien me explique cómo se puede tardar tanto para llevar una rpt

a sus dimensiones técnicas y al volumen de medios humanos y materiales empleados en la misma la inspección de trabajo ha aplicado especial rigurosidad en sus actuaciones realizando visitas de oficio y recabando la documentación oportuna de las diferentes empresas

la inspección de trabajo tiene asignadas entre otras como se ha dicho también las funciones de vigilancia y control de la normativa de prevención de riesgos laborales y de las normas jurídico técnicas que

en la obra del estadio de san mamés viene interviniendo desde el año dos mil once también se ha mencionado

representante como dijo el consejero las inspecciones realizadas son exhaustivas

actas de designación de coordinadores de seguridad y salud actas de cada reunión de coordinación anotaciones realizadas en el libro de incidencias carta de adhesión al plan de seguridad de la obra nombramiento de responsables de seguridad

información de riesgos del puesto de trabajo autorización para el uso de máquina y herramienta justificante de entrega de equipos personales de prevención a cada trabajador

examen de condiciones materiales de trabajo de contratos de trabajo de recibos de pago de salarios de justificantes de encontrarse al corriente en el pago de cuotas a la seguridad social consulta a la base de datos de la tesorería general de la seguridad social por tanto

tanto en materia laboral como en prevención de riesgos laborales

en compañía de dos subinspectores de empleo han girado visita específica con la finalidad de realizar el control de empleo y verificar si existen horas extraordinarias en la obra y por tanto el exceso de jornada y en su caso ratificar o no lo señalado en el artículo de prensa

evidentemente lo ideal sería que todas y cada una de las empresas intervinientes en la obra cumplieran la normativa vigente y en este caso parece que tres

no lo han hecho nos parece fatal y por eso el gobierno vasco por medio de la inspección de trabajo ha actuado y ha abierto los correspondientes procedimientos que se hallan en fase de investigación pero insistimos tres de las sesenta y siete no es una mala foto

aunque por supuesto que lo ideal sería que todas cumplieran por lo tanto si de la conclusión de la investigación se desprende que ha existido vulneración de la normativa

a dichas empresas sanciónese de forma ejemplar

pero que quede claro que la mayoría de las empresas han sido escrupulosas con el cumplimiento de la ley por lo tanto debemos ser rigurosos con nuestros planteamientos basándolos siempre en datos objetivos tenemos que tener cuidado en no crear alarma social

y sin embargo nos hemos venido encontrando con instituciones públicas y privadas que no paraban de llenar espacio en los medios de comunicación con proclamas como que se traba a destajo que se trabaja a toda máquina para finalizar antes de los tiempos previstos

a costa de los trabajadores y a costa de sus derechos laborales

y así se está viendo en las condiciones laborales que soportan y que se han descrito no solo por mí sino por otros

así pues la pregunta que debiéramos hacernos en esta cámara probablemente no sea qué más podemos hacer porque poco hemos hecho sino si estaríamos dispuestos a aceptar para nosotros y nosotras para nuestros hijos y nuestras hijas las condiciones de trabajo que han venido soportando los trabajadores en la obra de san mamés

hasta qué punto la democracia representativa es tan eficaz o no lo es porque mientas aquí perdemos el tiempo en estos debates mientras nos

mientras décimos que hemos seguido trabajando entiendo es lo que le toca a gobierno decir la línea de trabajo que ha desarrollado la realidad es bastante tozuda y la realidad demuestras que ha habido gente trabajando con condiciones salariales penosas penosas tan penosas que no las aceptaríamos seguramente ni para ninguno de nosotros y nostras

y sin embargo lo que hacemos aquí es volver a la ceremonia del buenismo a decir lo que no se debe hacer lo que estaría bien que se hiciera pero aceptando y acatando que mientras tanto se siguen dando esas situaciones para nosotros y para nosotras para euskal herria bildu la respuesta es clara no de ninguna manera se pueden aceptar esas condiciones porque ninguna instalación o infraestructura por muy aceptada que pueda ser socialmente por muy

puede justificar la conculcación sistemática de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y parece ya una evidencia que ahí

por qué este punto la mesa ha decidido separarlo del punto séptimo dado y una vez escuchadas las intervenciones tanto del proponente como de los representantes cuando han hablado del carácter general

como digo no entendemos por qué se ha disgregado este punto del otro porque en el fondo todos hemos hablado de no generar un islote con lo que es san mamés sino de generar una dinámica de protección y de buen uso del dinero público y de protección efectiva de los derechos de trabajadores y trabajadoras que es

y que es el punto que da un corolario o que da una lectura más general a esto mismo pero como digo nosotros en ese punto vamos a proponer bastantes medidas concretas y entre ellas

las contratas y las subcontratas estén obligadas a aplicar el convenio colectivo de construcción y obras públicas del territorio y que incluyan también las cláusulas precisas

cuando vemos lo que les ha pasado y lo que les está pasando a algunos trabajadores y trabajadoras en obras que van financiadas por dinero público porque no se puede poner dinero público

y lo que se debe hacer en términos de respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y luego durante dos años ha transcurrido más de dos años mirar para otro lado porque eso es lo que parece que ha pasado aquí

acceder a sus testimonios nosotros lo hemos hecho y nosotras lo hemos hecho y no es en absoluto difícil conocer

como en algún caso incluso ante la inspección de trabajo y sin embargo durante todo ese tiempo nos hemos

eso sí mostramos una tranquilidad pasmosa en comparación con la aceleración vertiginosa que algunos tuvieron para ocupar su trocito de palco en la inauguración de dicho estadio

y estamos de acuerdo con que se hable así y nosotros hablamos y nosotras muchas veces igual lo que habría que hablar es de qué tipo de empleo estamos hablando porque igual no estamos de acuerdo en el mismo tipo de empleo porque a nosotros no nos vale el empleo sin derechos no nos vale el empleo dónde a través de los mecanismos de subcontratación miramos para otro lado para que empresas que no son adjudicatarias directas puedan contratar con convenios que no son el del territorio y por tanto con condiciones laborales precarias indignas que como he dicho antes no aceptaríamos ni para nosotros y nosotras ni para nuestros hijos e hijas una realidad bastante sangrante y lacerante

los derechos laborales de las personas los trabajadores supongo que en eso estamos de acuerdo todos ni son un ente ajeno a nosotros por lo menos a mí no lo son

si las personas son lo primero y eso es algo que también se dice muchas veces en esta cámara sus derechos y en este caso los laborales entiendo que habrán de estar por encima de los márgenes de beneficio de unos y las urgencias de otros y si no que contraten a más personas con el convenio territorial de bizkaia para que no tenga que haber ni horas extras ni subcontratas

mucho más precarizadas que las del convenio sectorial de bizkaia

el análisis exhaustivo de las condiciones mismas porque más laberínticas se producen

porque somos muchos y muchas probablemente la mayoría y probablemente también la mayoría de esta cámara no es por tanto una posición confrontantiva al menos en esto que voy a decir los que

masa de seguidores del athletic los que damos más importancia a los derechos de los trabajadores a los derechos de las personas que están construyendo ese nuevo campo que a las premuras que a las goteras o que a las ansias de determinados elementos de esta sociedad que tienen una celeridad como he señalado antes increíble para ocupar o para exigir no sé si les corresponde o no su espacio en el palco de san mames pero que sin embargo no tienen esa misma diligencia

a unas condiciones de trabajo vertiginosas mila esker eskerrik asko matute jauna erantzunen txandara pasatuz

a los grupos que han firmado esta enmienda de transacción incluido el grupo popular que efectivamente la ha firmado y a los grupos que finalmente vayan a votar a favor de esta iniciativa que creo que es muy oportuna muy

esta iniciativa no crea alarma lo que crea alarma han sido las condiciones laborales que han padecido diferentes trabajadores decenas de trabajadores

de las obras de san mames y por lo tanto nuestra obligación no es venir aquí a hacer la rosca al gobierno vasco sino denunciar las injusticias allí donde se producen y la señora llanos que parece

ha venido a decir que denunciar los abusos está bien pero también debe reconocerse que las administraciones están actuando es que las administraciones tienen que actuar es que es su obligación es que la inspección de trabajo tiene que actuar no es un regalo que nos realiza el gobierno al resto de los ciudadanos es su obligación y evidentemente

se han venido haciendo cosas y las administraciones están actuando no lo suficiente porque ha habido situaciones de esclavitud

no pensamos nosotros en absoluto que sea una buena foto yo creo que es una foto muy mala

muy negativa una foto que no nos podemos permitir que la euskadi del siglo veintiuno solidaria sostenible y todo lo demás no se puede permitir

explotados durante largos meses y la inspección de trabajo del gobierno tenía que haber actuado de manera más diligente para evitar que esos hechos se produjeran algo ha hecho

algo ha hecho efectivamente ya lo explicó el consejero pero no lo suficiente porque se han producido situaciones de esclavitud situaciones injustas situaciones de abusos laborales y la obligación de los grupos parlamentarios creo yo incluso la obligación del propio grupo parlamentario que apoya al gobierno no creo que sea venir aquí a hacer la rosca

tres empresas son muchas empresas un solo abuso laboral es mucho pero es que se han producido se han producido decenas y se decía que no hemos dado datos bueno datos son las jornadas de doce horas siete días a la semana novecientos euros al mes situación padecida por varias decenas de trabajadores no tengo los nombres de los trabajadores pero han sido decenas de trabajadores los que han padecido esta situación en los últimos

es denunciarlo la interpelación señora arregi no era una curiosidad de upyd

hecha en la cámara que es donde tiene que hacerse en el parlamento vasco a esto nos dedicamos nosotros a observar qué es lo que hace mal el gobierno para denunciarlo

y por lo tanto ya digo esta moción no crea alarma es muy oportuna es muy necesaria y en todo caso señor matute no es una pérdida de tiempo no es una pérdida de tiempo porque en ese sentido podríamos pensar

relacionada con este asunto que luego debatiremos también es una pérdida de tiempo en fin estamos para esto estamos para presentar este tipo de iniciativas para denunciar los hechos

insisto es una moción muy oportuna muy

no nos podemos permitir mirar para otro lado no nos podemos permitir mirar para otro lado y puesto que nosotros no miramos para otro lado presentamos esa interpelación

sino por obligación porque pensamos que estamos para eso por eso presentamos aquella interpelación y por eso hemos presentado esta moción

agradezco que creo que el conjunto de los grupos va a apoyar

gracias de nuevo señora presidenta bien señor maneiro

que el señor consejero esté de acuerdo porque vamos creo que el control

le he sometido cuando estaba en otras responsabilidades no es precisamente de los de hacer la rosca

me da lo mismo quiero decir me da lo mismo yo lo que creo es que hay que ser riguroso creo que hay que ser riguroso

en absoluto lo que sí creo que debemos ser rigurosos

en ese sentido es que lo que no podemos hacer es decir que no se hace nada o que se mira para otro lado eso es lo que creo que sí genera alarma pero genera alarma y nosotros mismos somos los primeros que tenemos que ser responsables porque nosotros representamos a los ciudadanos

que nosotros lanzamos es que no controlamos lo suficiente y que desde aquí no controlamos al gobierno lo suficiente porque no se hace nada y se mira para otro lado en cualquier situación

en cuestión porque nuestra propia labor es la que se está poniendo en cuestión

que tres empresas no cumplan las condiciones eso es alarmante eso es sancionable y eso desde luego tiene que vigilarse tiene que ser sujeto a inspección

en caso de que se cumpla poner las sanciones y después vigilar el cumplimiento de esas sanciones y que esas situaciones no vuelvan a suceder yo estoy totalmente de acuerdo con usted y que un solo incumplimiento como en cualquier índole de la vida un solo delito ya genera alarma sobre todo para el que lo sufre

de acuerdo con usted me parece perfecto el que presentase la interpelación

ahora se ha presentado esta moción y hemos podido llegar a un acuerdo que sobre todo esperemos que se cumpla y ahora me voy a referir a bildu bueno una ya está acostumbrada la verdad que ya hay cosas que no sorprende esa

de que todos los demás pobres mortales somos adoptamos una postura buenista que lo que presentamos no sirve para nada y los que están en posesión de la verdad de la legitimidad y de la utilidad en sus iniciativas es bildu pues mire

como solía decir mi abuela para usted la perra gorda

pues muy bien pero mire la iniciativa del dos mil once quien la presentó fue ea que ahora está ahí sentada quien la presentó fue ea no sé para qué la presentó si es una iniciativa

absolutamente para nada pues la verdad no sé para qué la presentó

como en casi todos los órdenes en los que se refieren para ustedes

la denuncia es suficiente además también le digo una cosa y eso desde aquí creo que se lo tenemos que hacer llegar creo que es importantísimo

en los órganos que tienen que actuar porque además los sindicatos están para eso para velar por el cumplimiento de las condiciones laborales

antes de ir a la prensa que después pueden ir por supuesto donde tienen que ir es a la inspección para que se ponga coto a eso porque yo estoy de acuerdo con usted

que todos los incumplimientos tienen que sancionarse pero cuando se comprueban

la mera denuncia va uno llega a una comisaría una inspección da igual dónde

ya ha pasado por qué porque lo digo yo porque lo dice bildu que claro teniendo en cuenta que son los

normal pues no las cosas se denuncian se investigan se prueban se ve qué ha sucedido

se ponen sanciones y cuando están implicados los derechos de los trabajadores

para que no vuelvan a suceder y se vigila que se cumplan esas sanciones y se vigila

comportamientos porque cualquier vulneración de los derechos sean laborales o de otro tipo es absolutamente grave y deben sancionarse nada más y muchas gracias

reiterando lo que decía al principio nosotros sí creemos que es oportuna la iniciativa porque es que no sería de recibo que unas informaciones como las aparecidas en prensa no tuvieran un eco

y en segundo lugar para nosotros como grupo socialista porque es que la iniciativa también se prestaba a que sacáramos una cuestión que estaba pendiente que es la que

que es la relación de puestos de trabajo yo agradezco mucho al señor consejero que me vaya a explicar por qué se necesitan tres meses

de darnos la información que se precisa cuando uno la requiere y demás sin embargo debo decir

de modelos de democracia representativa participativa este es un ágora de debate de análisis

desde luego señora llanos para nosotros no es meternos con el gobierno yo le digo que nosotros no venimos a meternos con el gobierno pero sí a tratar de hacer

control impulso al gobierno claro un asunto como el que traemos ahora aquí que habla de la inspección de trabajo que por supuesto nadie ha cuestionado su trabajo su servicio su eficacia y sus funciones nadie las cuestiona claro que habrá todo una relación de intervenciones lo que estamos hablando es que se está revelando que ante un estado de cosas que se ha detectado que solo es la punta del iceberg usted dice que

no cumplan a mí me parece intolerable pero no alarmante eso está bastante en el día a día y seguro que si se hurga más se buscan más anomalías porque es verdad

los protocolos y las obligaciones que existen documentales son extensísimas hasta tal punto que no es fácil cumplir con todas de manera que solo por cuestión de bulto

que esas explicaciones sobre por qué se tarda tanto en aprobar una rpt yo las agradezco de antemano pero creo que este habría sido un gran lugar para hacerlo y por qué

a uno le da pie a pensar de que es un problema presupuestario se ha fundido la viruta de este presupuesto y esto hay que llevarlo al presupuesto que viene entonces aunque esto es un juicio apriorístico

pero por eso digo que sería muy conveniente que esas explicaciones sobre temas que aquí se traen y sobre los que se dilucida se planteen aquí y se traten aquí para saber realmente cuáles son las posiciones oficiales porque seguro que lo que me transmite el consejero es muy creíble muy verosímil y

pero es que creo que lo conveniente sería que esta cámara sus señorías enteras

misteriosa o de la alguna naturaleza que no permite ser publicada y creo que aquí todos los asuntos deben de ser tratados con luz y taquígrafos

todos compartimos la necesidad de exigencia del cumplimiento riguroso de la normativa laboral yo creo que en eso no hay ninguna duda y yo no he puesto en duda señor maneiro

quizá no lo he explicado bien o ha sido un problema de traducción con lo que no estábamos de acuerdo

la interpelación diciendo que no se había hecho nada en eso es en lo que no estamos de acuerdo y por eso

en la interpelación y por eso le hemos dado datos hoy también cuando hemos estado discutiendo esta moción por supuesto que el tema es grave se está investigando y se ha dicho

que se traerá aquí la información si es que los estimamos pertinente por eso creíamos que

por lo menos a esperar hasta que dichos informes estuvieran finalizados pues que podría haber quedado ahí

en su pleno derecho y puede presentar cuantas iniciativas estime pertinente lo que tenemos también muy claro

sancionar y también de forma ejemplar para que no vuelva a ocurrir en cuanto al señor matute

y que ha hablado de empleo del palco de san mamés en varias ocasiones de las goteras

el palco y las goteras que yo sepa la asamblea del athletic fue la semana pasada

y el tema del empleo hemos tenido ya un pleno monográfico hablando de empleo y para tener tantas ideas lo que no entiendo

y así podríamos haber tratado los temas que usted le parece

de san mamés respecto a la rpt señor itxaso como usted bien sabe y sino

en la legislatura anterior le podrán explicar sabe que requiere de una negociación colectiva

a esos acuerdos que requiere unos informes y si tan fácil hubiera sido y ustedes lo hubieran dejado cerrado

de la inspección de trabajo ni de la de lanbide estarían sin hacer porque si tan fácil era lo hubieran hecho supongo de todas formas el compromiso del gobierno es que ya sé que usted ha hablado de julio y ustedes pedían en su enmienda

las informaciones es que para finales de noviembre va a estar pero para cubrirnos hemos preferido poner un plazo

en este hecho de la rpt y usted y sus compañeros de bancada que tuvieron responsabilidades de gobierno se lo pueden explicar cómo es todo el procedimiento para poder aprobar una rpt

porque creemos de verdad que todos estamos de acuerdo en que se ha de ser riguroso en el cumplimiento de la normativa laboral

incumplimientos también esas sanciones han de ser ejemplares besterik ez eskerrik asko

creo que no es la primera vez que digo que ya me molesta a mí ser portador de malas noticias señora arregi

los deseos de que sean aprobadas por unanimidad pero nuestro grupo no va a apoyar esta iniciativa se va abstener y lo voy a explicar

lo voy a volver a explicar usted nos dice que si somos portadores de tantas ideas por qué no las hemos puesto se lo he explicado con claridad lo vuelvo a hacer

más que ideas iniciativas para poner aquí porque lo que yo he hecho no ha sido entrar en lo concreto

al sentido y al uso que de las decisiones que este parlamento hace tienen

las constructoras las que están señaladas muchas veces por tramas nada éticas tienen para no sentirse sometidas ni obligadas a lo que en este parlamento decidimos eso es lo que intentaba hacer en esta intervención en cualquier caso

que atenerse al tenor literal de lo dicho usted ha señalado que si lo que

quién lo tiene que estimar pertinente quién determina que es lo que tiene que venir a este parlamento lo ha dicho literal

de apropiarse de lo que es esta cámara sí se lo digo así como lo siento tal cual y

no que sea inapropiado y que la decisión que se pudiera tomar aquí era buenista porque parece que ante decisiones tomadas con anterioridad y

las conclusiones o las actuaciones no se han ajustado a la realidad

que no les concedo ningún carácter buenista en sus iniciativas para con los de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras ni buena parte de los trabajadores y trabajadoras por tanto no se incluya

y no me quedo con ninguna perra gorda si quiere ser ajustada a la realidad sepa que esta iniciativa que es la del dos mil once la hizo aralar no eusko alkartasuna

esta iniciativa del dos mil once que firma aralar el partido socialista y eusko abertzaleak

de mucha mejor manera lo que puedan ser irregularidades en las grandes obras con dinero público

a través de las cadenas de subcontratación haya seguido vulnerando los derechos de los trabajadores y trabajadoras sometiéndoles a jornadas esclavizantes esa es la realidad por tanto no le planteaba ninguna cuestión y sí le diré una cosa no se trata solo de recoger la primera denuncia que viene al vuelo si es que si se pasea por san mamés

usted vera cómo las jornadas de trabajo son interminables verá como los bares tienen que hacer acopio de provisiones para tener

de preguntarles a los trabajadores cuáles son las condiciones laborales a las que están sometidos eso es tan sencillo que no necesita que nos agarremos a ninguna denuncia para hacerlo

señalaba antes que este debate es un debate delimitado y que no se puede decir aquí

por ejemplo que en el ayuntamiento de bilbao en agosto se pidió al representante municipal encargado de esta cuestión que hiciera públicas las condiciones laborales de los trabajadores de san mamés barria lo solicitó eh bildu a día de hoy

de que también por su parte vamos a encontrar discursos sentidos y hondos sobre la necesidad de dignificar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras

sustancia en cero y yo no digo que traer esta iniciativa sea una pérdida de tiempo no lo digo es más

a veces a esta cámara no se le hace el caso que se le debiera hacer por parte de las grandes empresas ellas sabrán por qué se sienten tan blindadas porque no seré yo quien diga que en caso contrario

sigan explotando a trabajadores en condiciones salariales no ya ínfimas sino de denigrantes para toda condición humana

muchas gracias señora presidenta señorías en las últimas semanas

vasca de educación presentó ante la sociedad las intenciones del gobierno vasco de acometer una modificación de los currículum

curriculares para la enseñanza básica nos habló y lo hizo a través de los medios de comunicación antes de comparecer en la comisión del parlamento vasco

de que el gobierno vasco estaba trabajando con la comunidad educativa para elaborar

para la elaboración y desarrollo del marco del currículum vasco para la educación básica nosotros interpelamos a la consejera

de conocer cuáles son sus explicaciones en comisión hace pocos días nos preguntamos y queremos hoy hacerlo aquí en

hoy no se enfrenta a problemas más importantes nos preguntamos y lamentamos que hoy no esté aquí la consejera

nuestro sistema educativo en esta legislatura si realmente cree que el gran debate de la legislatura tiene que ser devolvernos a los tiempos

sobre los diseños curriculares que tienen que definir

cuáles son las competencias los contenidos que tienen que estudiar los jóvenes

y los niveles a alcanzar en cada una de las etapas educativas definir los contenidos es algo que es muy importante y tratar de modificar los contenidos los decretos curriculares sin haber hecho una evaluación previa de cuáles son los problemas

con los últimos decretos que se aprobaron en dos mil diez y plantear además una modificación que no reúna un consenso suficiente es

la educación vasca a la confrontación política basar el consenso en que determinados agentes educativos que promovieron

absolutamente ideologizados desde las patronales de las ikastolas privadas

creo que engañarnos y hacernos trampas en el solitario una iniciativa además que según la consejera pretende ser no la que defina las nuevas competencias y los contenidos en la escuela sino que pretende ser una respuesta al rechazo de esta comunidad

de diseñar decretos que traten de ir en contra de las normativas básicas de las leyes básicas que se aprueban en las cortes generales

creemos que es importante volver a incidir en este debate porque tenemos que poner de manifiesto nuestra preocupación de que

de nuestro sistema educativo se empeñen en imponer

la carga ideológica y poner la educación al servicio de la ideología nacionalista tratar como se atisba ya en los primeros trabajos de los planes presentadospor el gobierno que se quiera imponer además una euskal herria no en el término y en la acepción cultural y lingüística

el concepto de euskal herria de los siete territorios algo como una unidad política que

de acercar como dice el propio texto acercar la realidad nuestra realidad como pueblo a nuestra realidad político y administrativa nos parece que es una ofensa también y así se lo han manifestado ya las autoridades navarras a la propia identidad

se quiere imponer como se lo dijimos en comisión una euskal herria prefabricada a medida del nacionalismo que no respeta a nuestra historia sino todo lo contrario que trata de construir un imaginario adulterado tergiversando

confundiendo supuestos ideológicos con la realidad desde el partido popular hoy traemos esta moción porque queremos defender un sistema educativo

hoy se ocupe de los retos que tiene la calidad de nuestra escuela que se ocupe de incorporar las nuevas tecnologías de atender la diversidad

que se ocupe de resolver los problemas de competencias al término de la educación obligatoria superar los retos del fracaso escolar también no vale con compararnos siempre con andalucía para decir oiga en estos

que andalucía no vale con eso tenemos que saber exactamente a donde queremos ir sistema educativo queremos y más allá de las competencias necesitamos un sistema educativo que eduque en valores y que además de pensar en la calidad y en el futuro de los jóvenes busque la excedencia

pero que también sepa

una escuela que tiene que pensar que tenemos que educar a los jóvenes

que queremos un sistema educativo que respete

que sea respetuoso con lo que somos con nuestra historia que sea una educación

también eduque en el espíritu crítico que rechace el pensamiento único nacionalista en la escuela eso es lo que necesitamos y creemos que

con este planteamiento con este proyecto el gobierno va exactamente en la dirección contraria creemos que no es sostenible hoy en una democracia en el siglo veintiuno tratar de adoctrinar desde la escuela eso no es razonable hoy en día tenemos al revés que caminar justo en la dirección contraria por eso nosotros a través de nuestra moción pedimos que este parlamento inste al gobierno a respetar el marco jurídico existente que el departamento de educación del gobierno no se dedique a poner palos en las ruedas

a nuestros marcos jurídicos y a las normas básicas que se respete

buscando el consenso más amplio posible el consenso más amplio posible no es buscar acuerdos solo

mayoritarios efectivamente necesitamos también que

pero no basta con buscar consensos ficticios creemos que es posible abordar

desde acuerdos amplios cualquier modificación que tenga que ver con los diseños curriculares es muy importante que la consejera no solo venga a decir que no va a modificar nada si no hay un acuerdo amplio es muy importante que tengamos su compromiso claro de que los diseños curriculares que afectan

a la ideología en la escuela no se vean en este momento controlados por los agentes

ilegales los tribunales promovieron

que se habían cometido ilegalidades

por esta cámara usted ahora emprende una modificación en la dirección contraria nosotros esperamos que no nos devuelvan a los tiempos de la confrontación como le dijimos en comisión

nosotros necesitamos una escuela abierta no encerrada en sí misma creemos que euskadi necesita una escuela que mire al futuro no que trate de tergiversar lo que somos como país no necesitamos una escuela que trate permanentemente de fomentar

separadas y contrapuestas creo que tenemos que educar a los jóvenes vascos también en la verdad

saber que la escuela tiene de verdad que comprometerse en la defensa de la verdad y de esos valores que nosotros hoy

hoy los socialistas vascos no podemos transar nuestra posición con ninguna otra fuerza política del hemiciclo lo que nos corresponde es aclarar

ante dos cuestiones muy relevantes que el gobierno vasco ha conectado sin razón ni utilidad alguna son estas nuestra oposición

nuestra oposición a la propuesta de modificación del curriculum vasco propio y vigente desde dos mil diez unas cuestiones ambas mezcladas

quede claro que no queremos reválidas ni la doble vía en cuarto de la eso

ni la desaparición de la educación para la ciudadanía ni la forma que adopta la fp ni la pérdida de competencias de los consejos escolares

ni el tratamiento de la religión con valor académico mucho menos queremos la pérdida de competencias en nuestra capacidad auto organizativa y en tantas otras cosas pues bien señorías ninguno de estos problemas graves tienen que ver absolutamente nada con el desarrollo curricular

como del gobierno vasco porque el curriculum que prepara

y no vale porque en todo caso será un decreto no vale porque nada tiene que ver con los asuntos graves de la lomce

y desde luego no vale porque el propio documento heziberri dos mil veinte dice que tiene que esperar a los reales decretos para poder cerrar

nos separa también de la posición del pnv hoy el hecho de que pretenda salir de este debate haciendo mutis por el foro

de una ley de educación que nos venía anunciando era para la próxima legislatura así que

qué pretende hacer el gobierno vasco en relación a estas dos cuestiones que ha vinculado sin tener nada que ver como incluso se admite entre aquellos

va a recurrirla qué va hacer con heziberri a qué viene esta modificación curricular

la educación vasca tiene hoy deberes ineludibles y está totalmente quieta no avanza porque resistir no es bastante porque el mundo se mueve y nuestra distancia con el mundo se agranda la educación vasca

pero no es excelente hay mucho terreno para avanzar la excelencia es el terreno solo dejamos atrás un doce por ciento

es marginación solo un doce por ciento y nada menos que un doce por ciento hay que reducir esa cifra la equidad y la calidad van juntas y nuestro desafío ya no es el acceso universal a la educación

la completen con éxito por eso la evaluación diagnostica para eso la evaluación diagnóstica

de la mejora de un cinco por ciento para cada tramo en la barra de conocimiento no sabemos todavía si el gobierno actual ha asumido ese compromiso

con las ciencias estamos bien en lectura

va el gobierno vasco a plantear más planes con respecto a los existentes eso sería trabajar en lo real qué va a hacer con el trilingüismo por cierto pactado en nuestro acuerdo político qué va a hacer con la formación del profesorado en inglés de la que ha reducido hasta un noventa por ciento

del dos mil doce qué va a hacer eso sería trabajar en lo real

y a nadie se nos ocurrió decir que no era planteable aquel objetivo hoy tenemos un diecisiete por ciento de profesorado capacitado para impartir inglés eso sería política educativa real

de la que no sabemos absolutamente nada y los centros tampoco en todo este año eso sería política real y qué se nos ofrece

una reflexión teórica tremendamente vacía de contenido una metodología a modo de consultora en la que se ha retirado efectivamente la referencia étnica

por cierto sus verdaderos propósitos en la exposición de motivos de su ley preservando no obstante como en este caso su verdadera intencionalidad no hay nada

de lo que debamos hacer en la educación vasca que no se pueda abordar desde nuestro actual currículum absolutamente nada a qué perder tiempo y dinero entonces porque sabe el gobierno lo que le va a costar esta operación esta operación cuesta dinero esta operación supone recursos económicos qué es heziberri dos mil veinte pues en su versión más inocente

una metodología retórica que con palabras de consultora nos va avanzando nos dice cómo hay que hacer o qué habría que hacer

lo que siempre ha venido haciendo la administración vasca sin contarlo eso en la versión más inocente es decir reuniones y más reuniones más reuniones de contraste las aportaciones esa es la versión más inocente de heziberri dos mil veinte

pues la versión más ajustada es clarísimamente la unión de los nacionalismos de la euskal herria de los siete territorios algo que incluso se llega a tipificar como vinculante en la medida en que sea voluntariamente

señorías vinculante para francia vinculante para navarra si es que lo asumen voluntariamente

no hay más que ver recientemente hemos visto el proyecto de educación diferenciada que se asumen voluntariamente es un proyecto americano pero hay centros

las ikastolas de francia y las ikastolas de euskadi estén trabajando en el mismo currículum ya tenemos eso no vamos a volver a dar más vueltas

para fingir que se opone el gobierno

habiendo aportado la respuesta más débil la más tenue de todas las administraciones que no son del pp lo cierto es que podemos llegar a empezar a pensar que es que a este gobierno no le repele tanto la lomce y lo digo sin acritud

por qué porque mire tenemos religión hasta en el bachillerato desde ayer cuando

porque la concertada es más referente para este gobierno que la pública una cuestión absolutamente contra la modernidad porque señorías el tratar de decir constantemente

eso solo se puede lograr con las reválidas por lo tanto en fin para qué más

pues para ganar tiempo porque no da tiempo ahora para abordar la ley para ganar tiempo y para qué más

de euskal herria el currículum unificado que se nos dice

la exposición es clara el suelo común la utopía por fin hecha realidad

y eso qué es qué consigue el gobierno vasco con eso la unión de los nacionalismos la fortaleza de la unión de los nacionalismos pero esa fortaleza es la debilidad porque la unión de los nacionalismos es el enfrentamiento en esta comunidad

que es diversa por su propia naturaleza y plural entre el nacionalismo y el no nacionalismo

y para qué pues dice como se nos dijo en comisión para vivir en euskal herria y en el mundo

ya vivimos si es que somos vascos somos los de la euskal herria del estatuto de gernika euskal herria o país vasco el pueblo vasco

ya vivimos en euskal herria ahora lo de vivir en el mundo es lo que empieza a suscitarnos algunas dudas porque yo creo que el gobierno vasco debería ser consciente

enfrentarnos a un futuro global diferente que tiene que luchar contra el desempleo que tiene que luchar contra la pobreza y que para hacerlo necesita

la empleabilidad la capacitación y el conocimiento de todas sus gentes por lo tanto no perdamos tiempo no perdamos recursos económicos no estemos constantemente dando vueltas

oiga avancemos reaccionemos tenemos que darnos cuenta de que los desafíos del mundo son diferentes por tanto

en eso el grupo socialista estará con usted señora estará con este gobierno en la retórica vacía

creo que la moción planteada por el grupo popular se queda muy corta

claramente insuficiente porque lo que esta moción

lo que se plantea en esta moción es que el gobierno vasco respete el marco jurídico existente y la legislación básica en materia educativa

al gobierno porque creo que el gobierno vasco está en la obligación de cumplir y respetar el marco jurídico existente y la legislación básica en materia educativa

incluso defenderlo en esta cámara teniendo en cuenta que nos gobierna quien nos gobierna pero creo que se queda corto

se añade a eso la búsqueda de un amplio consenso que quizás sea necesario pero que en todo caso es suficiente para defender la mejor educación posible en euskadi y por eso digo que se queda corta y por eso hemos presentado la enmienda que nosotros hemos presentado lo que pretende añadir esto que propone el grupo popular pues

parlamento al departamento para que descarte cualquier propósito de adoctrinamiento ideológico e imposición de los postulados y diría yo imaginario nacionalistas que creo que comparte el grupo popular pero que no lo ha señalado en su moción

por eso digo que se queda corta esta moción y de ahí nuestra enmienda yo creo que en euskadi tenemos básicamente dos problemas en relación a este asunto tenemos un problema

que tenemos como consecuencia de que somos españoles y formamos parte del estado y somos ciudadanos españoles nos gobierna el pp como consecuencia de esto

y luego tenemos otro problema y es el hecho evidente de que nos gobiernan los nacionalistas y nos gobierna el partido nacionalista vasco por tanto tenemos el problema de la lomce y tenemos el problema

que es algo que han venido haciendo siempre que han podido gobernar incluso cuando no han gobernado casi también lo han hecho por lo tanto esos son los dos graves problemas en relación a la lomce nosotros hemos sido muy críticos

presentamos varias decenas de enmiendas parciales y finalmente votamos que no

se incluyeron en el texto definitivo en fin hemos venido dando explicaciones en el congreso de los diputados porque también participamos en esa ponencia para tratar de mejorar

para corregir sus fallos y a eso nos hemos dedicado en los últimos meses y hemos dado

para votar en contra no se revisa el modelo pedagógico mantenido en el tiempo y por tanto

de diecisiete subsistemas autonómicos lo cual crea problemas de financiación de igualdad y de evaluación se introduce la religión como evaluable

asignatura de educación para la ciudadanía y se plantea una mayor intromisión de las comunidades autónomas que nombrarán al director del centro

y control a los centros privados concertados lo que no deja de ser un favoritismo

nosotros hemos venido defendiendo que era necesario reformar la loe pero desde luego no en el sentido

la lomce es básicamente la loe con algunos cambios

reformada y nosotros pensamos que seguimos necesitando una nueva ley que trate de resolver los problemas educativos que siguen existiendo la lomce no mejora la selección y situación del profesorado

el requisito sine qua non para cualquier mejora educativa además el profesorado de los centros públicos tendrá menos autonomía para decidir asuntos que debería decidir

y la elaboración de itinerarios educativos dentro del marco legal y también pensamos que la separación por sexos no debería ser una práctica subvencionada porque

de coeducación además los centros concertados recibirán dinero público pero no serán evaluados ni controlados como los centros

y se consagran los diecisiete subsistemas educativos con su tendencia al alejamiento curricular dificultando además la movilidad geográfica de alumnos

renuncia también al espacio español de educación obligatoria y se maltratan las humanidades y las enseñanzas artísticas por lo tanto hemos sido muy críticos con la lomce y lo seguimos siendo en la lomce no nos gusta

no queda otra que hacerla cumplir y lo que debe hacer el departamento de educación es analizar seria y rigurosamente los errores del sistema

pero lo cierto y este es el segundo problema que tiene euskadi es que los propósitos de este gobierno son distintos el ejecutivo vasco el departamento de educación pretende la aplicación de una nueva vuelta de tuerca

ha impulsado pretende el adoctrinamiento ideológico

para convertirlos a todos en nacionalistas pretende impulsar y defender la gran euskal herria lo dijimos y lo décimos hoy también se pretende una operación política con objetivos políticos una nueva vuelta de tuerca para el adoctrinamiento ideológico para la defensa

del pueblo vasco para defender la gran euskal herria para inocular manipulaciones históricas para defender el expansionismo hacia el sur de francia y navarra y para producir más ciudadanos nacionalistas estos son los propósitos de este gobierno

cuando ha podido gobernar por lo tanto por eso digo que tenemos dos problemas

hemos sido muy críticos y que votamos en contra en el congreso de los diputados y aquí en euskadi

el propósito del adoctrinamiento ideológico de vendernos la gran euskal herria y de convertir a toda la ciudadanía en ciudadanos nacionalistas en ese sentido por eso decía que la moción planteada desde el grupo popular se queda corta

en el sentido de que únicamente defiende el cumplimiento de la normativa básica el cumplimiento de la legalidad vigente y defiende un amplio consenso cosa que no está mal pero que ya digo

el discurso del señor oyarzabal en relación a los propósitos del nacionalismo los compartimos nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

aukera lekuz kanpo daudenak eta egiarekin inolako zerikusirik ez dutenak a pesar de haber escuchado afirmaciones irresponsables injustas

eso es lo que algunos tratan de hacer desviar el debate y no entrar a debatir el fondo de la cuestión entendemos que este debate debiera ser constructivo comprendemos y aceptamos

no un debate destructivo en el que no hay alternativas ni propuestas bihar beteko da hilabete eusko jaurlaritza hezkuntza arloko eragileekin elkartu

todo lo que no ha hecho baina ez omen da hala ere argi geratu horregatik

al mismo tiempo de inacción y al mismo tiempo dice en su enmienda que actúa de forma precipitada en qué quedamos usted sabe que no es verdad ni lo primero ni lo segundo

una manera de comenzar a andar el camino a qué teme usted por qué trata de despreciar y de desviar la atención no será que usted fue incapaz

y se dedicó a los divertimentos como usted dice euskal herriari dagokionez

señor oyarzabal nuestro grupo no va a votar a favor de una iniciativa suya en la que se hable de legislación básica en materia educativa porque a la vista está que no entendemos lo mismo por legislación básica

en educación y en todo lo demás y en ese afán recentralizador les da igual pasar por encima de las competencias de otros en nuestro caso el estatuto de gernika que dice que es competencia la enseñanza en toda su extensión niveles y grados modalidades y especialidades a ustedes esto les da igual o lo que es peor les parece bien incluso

y nosotros por ahí no vamos a pasar y usted lo sabe perfectamente usted sabe que esta iniciativa tiene mucho más calado que el tema del consenso a la hora de elaborar o modificar el curriculum en la necesidad del consenso estoy de acuerdo con usted en todo lo demás en nada

además de ambiciosa y constructiva es mucho más integradora y entendemos que es aceptable por todos los grupos por tanto les pido
su voto a favor eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea